que nos acompañan representantes de las organizaciones no gubernamentales

siete de junio una interpelación al lehendakari sobre cooperación al desarrollo y para conocer los planes del gobierno en esta materia en esta época de crisis efectivamente ya había comparecido el directo de cooperación

retirada de los presupuestos conocer la opinión del lehendakari fue una iniciativa y esta también constructiva

sobre esta cuestión nosotros desde luego en esa interpelación no podía ser de otra manera en este tema nos comprometíamos a

el país vasco de nuestra buena historia en la cooperación al desarrollo y en la simple ejemplar

en esta materia hemos firmado una enmienda de transacción

político que apoya al gobierno pero nosotros la interpretamos y la formulamos como un apoyo al gobierno como darle desde el parlamento una clave desde esta cámara para que pueda actuar y para que tenga una referencia en positivo en la búsqueda de la no confrontación la búsqueda

de ayudarle también al gobierno en esta materia de darle con esta actitud una pauta yo creo que el gobierno

o incomodado independientemente de lo reflejado en el fallido proyecto de presupuestos sino a partir de ahora y con estas iniciativas y con estas

y alentado para trabajar en esta materia además

organizaciones no gubernamentales las personas los colectivos que trabajan en cooperación al desarrollo

pendientes que nunca de las referencias de las actuaciones de las iniciativas de los compromisos de las administraciones públicas en esta materia en la cooperación al desarrollo ayer mismo

la señora arriola presidenta de la coordinadora de ongd de euskadi

artículo titulado el bien común que decían cosas

interesantes y que ayudan también a la construcción de esta iniciativa y que también deben de servirnos de referencia en algún caso de guía

pequeño párrafo la solidaridad internacional nada tiene que ver con una

compromiso social y público estable en el tiempo con capacidad de salvar y mejorar vidas de construir una ciudadanía universal e incidir

interesante párrafo una buena idea

de referencia también para lo que tiene que ser esta iniciativa que presentamos

hablaba el otro día de ser realistas de ser

y nosotros lo entendemos y además lo compartimos tenemos que ser realistas y tenemos que ser conscientes de la situación y le pedimos que haga un esfuerzo que priorice y que en la medida de lo posible corte donde deba de cortar o donde

pero que en cooperación pues no se vea muy perjudicada se va a ver en cualquier caso pero

como parecía que podía ser en esa

nosotros decíamos que estábamos hablando de referencias no políticas sino de referencias éticas de referencias de solidaridad el lehendakari además

de la vigencia y la promoción de los derechos humanos y decía que estos constituyen una columna vertebral del edificio ideológico e instrumental de la cooperación para el desarrollo

otra vez de solidaridad de derechos humanos y esa para nosotros es la cuestión fundamental y nuestro papel motor vasco en relación con el motor de servir un poco de motor vasco de estímulo en relación con esta cuestión

y lo décimos ahora seguiremos colaborando para mejorar queremos ayudar al gobierno a que haga un enfoque realista de esta situación y en ese sentido por eso hemos

grupo socialista y con el grupo mixto upyd una enmienda de transacción una enmienda de transacción que consta de cuatro puntos el primero

plasmado en la ley vasca de cooperación y expresa su voluntad de alcanzar

volvemos también en el realismo de voluntad de alcanzar

estamos todos hacemos un segundo planteamiento que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en la ejecución presupuestaria del año dos mil trece mantenga un gasto equivalente al menos al cero coma cinco

habrá que analizarlo con rigor y efectivamente tendrá que

decíamos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en los próximos proyectos presupuestarios preserve la proporción de gasto en ayuda al desarrollo alcanzada en las últimas décadas de forma que cuando las circunstancias económicas lo permitan se pueda continuar el camino fijado en la ley vasca

transacción y décimos también que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a pactar

también entendemos que el gobierno tratará de hacerlo no nos cabe ninguna duda

una estrategia de materia de cooperación del desarrollo adecuada a los recursos disponibles a las áreas en las que se ha concentrado la ayuda a lo largo de los últimos años y a los ejes estratégicos de intervención con el objetivo de mantener el impacto

que es una iniciativa constructiva que es una iniciativa que no busca lesionar o socavar o la acción del gobierno sino al revés es una iniciativa que tiene componentes solidarios éticos

que tome las medidas y que las explique en el parlamento en cualquier caso vuelvo a decir es una iniciativa eveidentemente constructiva y de

en materia de cooperación al desarrollo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

ha sido para muchos pueblos instituciones y movimientos sociales de euskal herria y del mundo un signo de compromiso y solidaridad en el proceso de transformación social ciertamente la solidaridad internacionalista y los procesos de transformación de los últimos años han caracterizado la cooperación vasca que

teniendo como base la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres nazioarteko lankidetzaz aritzean

y por tanto se trata de la universalidad de los derechos humanos se trata de los derechos para todas las personas y no se puede limitar los derechos para mantener los privilegios

la pobreza supone la violación más flagrante de los derechos humanos y existe una corresponsabilidad global por parte de las instituciones de garantizar el bienestar de todas las personas y pueblos

un desmantelamiento paulatino pero acelerado de la cooperación vasca descentralizada y la desaparición de un gran número de organizaciones del sector que buscan cambiar radicalmente el modelo actual hacia otro más justo e igualitario este brutal

tiene una traducción humana una clara repercusión en materia de educación

participación en los asuntos públicos acceso al agua potable y sistemas de saneamiento lucha contra el hambre y sus causas en miles de personas que viven en situación de extrema pobreza y desigualdad en los países empobrecidos estos recortes suponen un frenazo a la capacidad transformadora de esta política que busca hacer frente a la pobreza y a las desigualdades

también se verán afectadas las iniciativas de nuestro entorno que buscan la sensibilización de la ciudadanía vasca para lograr un mundo más justo

muchas personas están perdiendo sus puestos de trabajo y los y las trabajadoras del sector están sufriendo un continuo deterioro en sus condiciones laborales en algunos casos bastante precarias estos brutales recortes que se vuelven a plantear en cooperación para la propuesta presupuestaria siguiente

un análisis elaborado por la propia coordinadora ahora cuando la crisis sistémica

en momentos como estos en los que la crisis civilizatoria que padecemos parece más latente se deberían mostrar los verdaderos valores de solidaridad internacionalista que han caracterizado a la cooperación vasca para poder continuar con su trayectoria en la lucha por un mundo más justo

las personas tienen que ser nuestra prioridad absoluta y a la hora de elaborar las políticas

que afortunadamente debido a la presión popular fue retirado pero que continúa con la misma política según hemos tenido conocimiento la política de cooperación es una política social

estos recortes son injustificables desde la perspectiva de ciudadanía global y solidaridad entre los pueblos la cooperación para el desarrollo constituye una política en sí misma

tampoco tiene que tener por objetivo la proyección exterior del gobierno vasco

al contrario se trata de una política de carácter estable y permanente fruto de la voluntad política de la solidaridad internacionalista basada en la justicia social además de lo mencionado anteriormente

en primer lugar la paralización y retroceso de muchos procesos de cooperación en muy diferentes países y con muy diferentes agentes sociales y políticos que definen una experiencia de treinta años de relaciones internacionales

que la cooperación traslada también a nuestra sociedad cogiendo fuerza mensajes peligrosos ante la crisis y sus consecuencias mensajes populistas que se traducen como primero los de aquí la cooperación es prescindible no es un derecho

otro grave problema es la ruptura del compromiso ético político y social con muchos procesos abiertos durante todos estos años en continentes como américa latina la solidaridad con las personas más vulnerables es irrenunciable acabar con la pobreza y la expulsión es posible y es una obligación ética y política para el cumplimiento de los derechos humanos

es imprescindible destacar una fecha cuatro de julio de dos mil doce día en el que el consejo vasco de cooperación aprobó una declaración institucional que decía textualmente lo siguiente apostamos por generar y mantener recursos estables y previsibles de financiación para el desarrollo sin renunciar a alcanzar en un futuro próximo el cero coma siete por ciento

no hablamos del cero coma siete por ciento que establece la ley hablamos del mantenimiento de recursos estables y previsibles de financiación para el desarrollo

sin duda el impacto del recorte presupuestario en cooperación será determinante para muchas mujeres del sur que verán retroceder tanto su desarrollo económico y personal como el de sus sociedades

procesos de lucha contra la pobreza y autonomía económica de las mujeres etcétera como muchas otras esto es una cuestión de voluntad política que atañe a los partidos a las instituciones

es posible generar los recursos necesarios para acabar con la pobreza estructural solo se necesita voluntad eskerrik asko eskerrik asko urrea

arratsalde on guztioi los socialistas defendemos que la cooperación al desarrollo es un elemento clave para avanzar

es una obligación de los países desarrollados para con aquellos a los que históricamente

naturales algo que por cierto seguimos haciendo países a los que hemos destruido sus formas tradicionales de organización económica y social sin ofrecerles alternativas la crisis económica está agudizando las desigualdades en el seno de los países desarrollados pero la diferencia entre ricos y pobres se hace mucho más visible en los países que se denominan en vías de desarrollo en cualquier caso lo que se constata es que en los países de pobreza endémica esta se extiende

en el mundo señorías hay hoy mil millónes de personas que pasan hambre

está amenazada los socialistas por tanto

en los últimos años en corresponsabilidad con los países con amplísimas capas desfavorecidas nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la cooperación al desarrollo no se convierta en chivo expiatorio de las actuales dificultades económicas y de las políticas neoliberales nuestro compromiso es con los mil millónes de personas que pasan hambre en el mundo

en este sentido la situación de esas personas exige que la cooperación al desarrollo vasca se mantenga al menos en los niveles alcanzados en los últimos años

de las dificultades que existen en este momento para alcanzar el cero coma siete por ciento de aportación a la cooperación en legislaturas pasadas conseguimos

y para alcanzar el objetivo tendremos que esperar a que las condiciones económicas

pero tenemos absolutamente claro que si ahora retrocedemos

en su comparecencia ante esta cámara el pasado seis de marzo no ya

se plantará como objetivo imposible sino llegar a los niveles de aportación

va a ser muy difícil cuando anunció los recortes el director de la agencia entre otros argumentos aportó

donde en este momento se ubica la agencia vasca de cooperación iba a mermar su presupuesto en un cuarenta por ciento

casi insultante decir que la cooperación debe restringir su presupuesto en el mismo nivel que la dirección de protocolo por ejemplo con todo el respeto por supuesto para las personas que se ocupan de esa labor los socialistas apostamos claramente por mantener el presupuesto de cooperación en los parámetros relativos de los presupuestos del dos mil doce una centésima más para ser exactos

esta mañana es decir apostamos por el cero coma cinco por ciento de los ingresos

del gasto que vaya a efectuar

por el gobierno vasco en este ejercicio señorías las dificultades económicas a la hora de configurar los presupuestos públicos no han aparecido en este ejercicio cuando el señor urkullu es lehendakari ocurre

prioridades que ponían el compromiso de los más desfavorecidos por encima de otras cuestiones

tienen que elegir recortes en cooperación en los mismos términos que los gastos de protocolo o considerar las políticas de cooperación como una más de las políticas sociales a priorizar además en esta cuestión tenemos un argumento añadido para mantener la aportación y es que en términos absolutos esta

no es una cantidad considerable en términos como digo absolutos

la política de cooperación al desarrollo no es algo retórico o que tenga que ver con la caridad para nosotros es una obligación

para avanzar en la igualdad en el mundo nuestro compromiso con la cooperación ha quedado claro como cuando hemos gobernado lo hemos demostrado con hechos durante el gobierno del lehendakari patxi lópez ese gobierno

porque estas como he dicho antes no son nuevas mantuvo los niveles de aportación presupuestaria a la cooperación por otra parte cumpliendo con las exigencias legislativas la agencia vasca de cooperación comenzó su andadura en la anterior legislatura y

se ha convertido en un instrumento plenamente eficaz para planificar coordinar gestionar ejecutar y evaluar la política de cooperación para el desarrollo la agencia ha desarrollado una planificación estratégica adecuada y ha definido intervenciones transversales y sectoriales además de coordinar

la calidad del enfoque y desarrollo de los proyectos implementados unido a la cantidad de fondos aportados y el consenso social que en la sociedad vasca

ha hecho de nuestro país un referente indiscutible a nivel estatal y europeo más de veinticinco años de buen hacer avalan a todos los agentes públicos y sociales implicados con la cooperación quiero en este momento felicitar a todos estos agentes por

por último reclamamos el consenso histórico que se ha dado en nuestra comunidad autónoma respecto a la cooperación un consenso entre

y el gobierno vasco para impulsar estas acciones que he comentado

en este apartado queremos por último hacer un llamamiento

que apoya al gobierno a que reflexione y corrija la deriva que ha emprendido en esta legislatura respecto a la cooperación al desarrollo vasca espero que entre todos

y a todas buenas tardes señor lehendakari digamos que la enmienda de totalidad que

partido popular resume perfectamente nuestra posición en esta materia la enmienda de totalidad que presentamos decía lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco

y a definir una ruta temporal para llegar al cero coma siete por ciento del gasto total

tal y como se recoge en la ley de cooperación al desarrollo

incorporado finalmente a la enmienda de transacción hemos llegado a esta enmienda de transacción que

popular y con el grupo socialista una enmienda de transacción que no es de apoyo al gobierno sino de exigencia al gobierno incluso de crítica al gobierno nosotros

lo que proponemos es que este parlamento se reafirme en su compromiso de solidaridad plasmado en la ley vasca de cooperación y exprese su voluntad de alcanzar el objetivo del cero coma siete por ciento del presupuesto anual destinado a programas de ayuda al desarrollo

a que en la ejecución presupuestaria del año dos mil trece mantenga un gasto equivalente al menos al cero coma cinco por ciento del total

a cooperación al desarrollo proponemos que este parlamento inste al gobierno en los próximos proyectos presupuestarios preserve la proporción de gasto en ayuda al desarrollo alcanzada en las últimas décadas de forma que cuando las circunstancias económicas lo permitan se pueda continuar el camino hacia el objetivo fijado en la ley vasca de cooperación

una estrategia en materia de cooperación al desarrollo adecuada a los recursos disponibles en cada momento nosotros no estamos en absoluto de acuerdo en que

al desarrollo en el fallido proyecto de presupuestos haya sufrido uno de los recortes más pronunciados de toda la administración casi un cuarenta por ciento nosotros no estamos de acuerdo con que se recorte la cooperación a la mínima oportunidad o con cualquier

razones presupuestarias no estamos en absoluto de acuerdo recortes que son recortes obviamente sociales ponen en riesgo las políticas de desarrollo que se están ejecutando desde hace años el riesgo no solo existe por lo tanto

de las que han estado en marcha durante años no podemos olvidar que con la financiación de proyectos de cooperación se pretende conseguir la mejora de los índices de desarrollo humano mejorar la educación mejorar la sanidad mejorar la seguridad alimentaria en fin hacer un mundo más justo que el actual

de personas son procesos largos que necesitan de un apoyo constante estable y permanente incluso en momentos de crisis económica

apoyo a la cooperación drásticamente en momentos de crisis es una muy mala opción que nosotros no compartimos en absoluto y que además provoca como aquí se ha dicho también pérdidas de puestos de trabajo en fin es por esto por lo que hemos firmado

transaccional lo cierto es que euskadi durante las últimas décadas se ha caracterizado por un compromiso muy fuerte muy meritorio con la cooperación es como para sentirnos orgullosos de lo que históricamente se ha hecho no podemos abandonar este compromiso político y ético un compromiso por cierto que nos beneficia también a nosotros

como personas y como ciudadanos lo que hay que hacer por lo tanto no es abandonar este compromiso sino mantenerlo y fortalecerlo ahora y en el futuro y cumplir

el pasado marzo quedó claro el compromiso histórico que el gobierno vasco mantiene con la cooperación al desarrollo así como su voluntad de continuar en el mismo sentido

la firma de un convenio plurianual con la coordinadora de ongs por importe de seiscientos nueve mil euros destinados a financiar las actividades de esta asociación

en la primera semana de legislatura es reflejo también del compromiso de este gobierno y del grupo que lo sustenta con la cooperación al desarrollo

que debía haber sido firmado a mediados de dos mil doce quedó pendiente en el debe del anterior gobierno

de que de no aprobarse antes del treinta y uno de diciembre del año pasado la coordinadora se hubiera visto con serios problemas para subsistir euzko abertzaleak tiene claro que no podemos obviar la situación económica actual responsables de cooperación del gobierno vasco y del partido nacionalista vasco se han reunido con la coordinadora de ongs de euskadi y con distintas ongs

desde el principio han tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo con total transparencia la comunicación y cercanía han sido una constante en la labor de los responsables de cooperación del gobierno del pnv y de euzko abertzaleak se les ha explicado la realidad sin tapujos

nos gusta pero a la que nos vemos abocados por la falta de recursos tenemos claro que hay que ser muy rigurosos en el gasto y no podemos gastar más de lo que tenemos

ahora bien dicho esto hay que poner en valor que a pesar de las dificultades el compromiso del gobierno vasco con la cooperación al desarrollo es meridianamente claro

así mismo es importante señalar que la totalidad de los compromisos adquiridos en ejercicios presupuestarios anteriores se mantendrán este hecho nos parece especialmente relevante porque en general los efectos de los programas de cooperación

por lo que nos parece imprescindible mantener con financiación aquellos proyectos comprometidos en ejercicios anteriores por otro lado y a pesar de que en un principio parecía que no se podría abrir la convocatoria del focad para el año dos mil trece tras la preocupación mostrada por las ongs el director de la agencia vasca de cooperación manifestó en la comparecencia de marzo

con cargo al presupuesto de este año a la menor disponibilidad económica y límite del déficit que todos ustedes conocen y del que hemos hablado en muchas ocasiones

parlamento se une que el gobierno anterior aprobó proyectos sin fondos

el desfase de casi seis millónes de euros lo cual también ha contribuido

la voluntad de alcanzar este objetivo del cero coma siete por ciento del presupuesto anual

está recogido en la ley de cooperación al desarrollo por lo que además de un objetivo es una exigencia legal que debemos entre todos conseguir según la ley se debería haber alcanzado el cero coma siete por ciento para el año dos mil doce lo cual no ha ocurrido como ya han expuesto también otros portavoces y como bien también recogía la propia justificación del partido socialista

el lehendakari ya asumió el compromiso firme de recuperar los montos dedicados a la cooperación a lo largo de esta legislatura y así lo recogemos en nuestra

respecto a las peticiones de mantener para la cooperación al desarrollo como mínimo

dos mil doce o ahora el cero coma cinco por ciento ya les hemos dicho que es imposible

o pueda pagar ni hipotecar ejercicios posteriores señor barrio reconociéndole su implicación personal con la cooperación por ejemplo con el sahara

que la moción que ha presentado es cuando menos sorprendente ya que el gobierno del pp en el estado ha recortado las ayudas a la cooperación al desarrollo en un ochenta por ciento en otras comunidades autónomas como por ejemplo cataluña no se pagan las cantidades adeudadas por proyectos aprobados esto es no se ha abonado lo ejecutado y aprobado

denuncia del partido socialista porque solo se había dedicado a cooperación al desarrollo

también en comunidades gobernadas por el partido socialista como andalucía se han producido recortes en las partidas destinadas a cooperación al desarrollo pero ese

siga siendo un referente en dicho ámbito como lo ha sido hasta la actualidad pero también creemos que todos los grupos somos conscientes de la menor disponibilidad económica

por lo que apostemos por llegar a acuerdos de mínimos teniendo presente que es importante alcanzar por lo menos las cantidades destinadas hasta ahora a la cooperación al desarrollo a lo largo de la legislatura sin olvidar alcanzar el cero coma siete

sí muchas gracias señora presidenta y brevísimamente desde el escaño yo le entiendo a la señora arregi realiza críticas en relación con la gestión en otros

yo soy parlamentario vasco y tengo que trabajar con los instrumentos que yo tengo y en ese sentido yo creo que tengo instrumentos para trabajar y pedir lo que yo pido en esta iniciativa

sustanciación de la interpelación yo le entendí al lehendakari yo le dije además

ayudarle y apoyarle y en esa filosofía no contenciosa es cuando es la que hemos firmado esta enmienda de transacción creo yo yo creo que el gobierno

al gobierno ha entendido la proposición no de ley y creo que

mantener en este momento una actitud política es más yo creo que le estimula incluso yo creo

que la podrá realizar yo creo que tranquilamente es decir hay de dónde sacar hay de dónde sacar para la cooperación al desarrollo

hay delegaciones vascas en el exterior que funcionan como embajadas

hay canales de etb que sobran hay posibilidad de reducir sociedades públicas empresas públicas

yo creo que hay de dónde sacar de ahí para trabajar en cooperación al desarrollo yo también entiendo que ponga de manifiesto eso es bueno que ha habido malas gestiones en gobiernos anteriores

problemas de gestión y no se produzcan esas disfunciones pero vuelvo a decir

es constructivo es de apoyar al gobierno es de estimularle para que una materia como esta que no es estrictamente política o jurídica sino que es ética y de solidaridad

que hemos mantenido hasta ahora muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

eskerrik asko desde euskal herria bildu consideramos que las políticas de las instituciones vascas

por una parte evitando las nuevas tendencias de la cooperación que parece que se nos viene encima y que tiene que ver con la privatización y la corporativización de la cooperación

de esta manera se está construyendo una nueva lógica de cooperación basada en las alianzas público privadas en las que las instituciones públicas las empresas transnacionales y las ongs trabajan conjuntamente

toda labor de incidencia política empoderamiento derechos humanos etcétera

en resumen no a las alianzas público privadas no a la entrada de las empresas en las políticas de cooperación

y por otra parte las instituciones vascas también pueden ser un referente impulsando y consolidando una política pública de cooperación con identidad transformadora

para una existencia digna basada en la ciudadanía universal y la corresponsabilidad global

incidiendo sobre sus causas estructurales políticas económicas sociales ambientales y de género que evite el mero asistencialismo y volcada en el acompañamiento de los sujetos de transformación

es decir que la cooperación debe acercar mucho más a los movimientos sociales acompañar los procesos de cambio de países verdaderamente comprometidos con la transformación social y apostar por una gobernabilidad mundial basada en la ciudadanía global y no en privilegios de estados poderosos

o proponer un recorte del treinta y seis por ciento y el

es imposible el cero coma cinco por ciento que decía cuando toda la oposición

se lo está diciendo va a salir adelante una propuesta menuda democracia voy a concluir utilizando un fragmento del manifiesto realizado por la asamblea de trabajadoras y trabajadores del sector de la cooperación y de ayuda al desarrollo como respuesta a la primera propuesta presupuestaria en la que se encuentran lab ela comisiones obreras ugt esk

brutal recorte supondría es injusto atribuir al endeudamiento público a los gastos destinados de cooperación pero es más injusto que nos olvidemos que las personas van primero y que deben ser el centro de las políticas públicas no los mercados o los bancos no podemos admitir que nos hagan elegir entre las personas de aquí o de allí frente a mantener el status quo de las multinacionales y las instituciones financieras

no es una limosna ni un mero acto de solidaridad sino de responsabilidad ciudadana y de compromiso con la justicia social y el bien común

en la práctica estas decisiones están suponiendo un deterioro para el avance del desarrollo humano equitativo y sostenible incidiendo en las condiciones de vida de miles de personas cuando caemos en discursos que priorizan nuestra ciudadanía con respecto a otros países

olvidamos que nuestros hábitos de consumo tienen incidencia directa en su situación olvidamos nuestro papel en el deterioro ambiental de su entorno olvidamos la deuda ecológica que tenemos con los países del sur olvidamos que muchas empresas les usan como mano de obra barata para fabricar los productos que consumimos

en definitiva olvidamos que nuestro modelo de desarrollo es responsable de la situación de vulnerabilidad de las personas empobrecidas

eskerrik asko señora arregi usted se ha quedado

en este debate una vez más el gobierno el partido que apoya al gobierno se han quedado solos

en un debate que tiene que ver con las políticas sociales en un debate que tiene que ver con la solidaridad en un debate que tiene que ver con principios éticos sociales

pero además usted señora arregi con todo el respeto se lo digo

no ha entrado para nada al fondo de la cuestión usted habla

el director de la agencia vasca de cooperación de recuperar los índices que dejó

pero no dicen cómo yo no sé si ya tienen ustedes la bola

que mejorando la economía ustedes van a poder implementar

este incremento a lo largo de esta legislatura yo no sé si ustedes pretenderán igual ponernos

al final de la misma yo lo veo muy difícil y se lo he dicho pero veo muy difícil alcanzar

en esa perspectiva de años y lo veo difícil desde el cero coma cinco que le estamos reclamando pero muchísimo más si bajamos al cero coma treinta y dos que es lo que ustedes han propuesto lo que de verdad le estamos nosotros planteando por parte del grupo socialista no es tanto esa discusión sobre números o no números sino es una discusión ideológica es una cuestión de principios

la cooperación al desarrollo como una política social más y entonces van a implementar el recorte

que se hace a otras políticas sociales o lo consideran como protocolo porque en estos momentos está dentro de lehendakaritza la agencia vasca de cooperación esa es la cuestión

resolver aquí como grupo que apoya al gobierno vasco

si la política es de cooperación son unas políticas sociales más o

hacemos tabla rasa como quitamos el cuarenta por ciento

a la agencia vasca de cooperación porque entra allí qué hubiera pasado si por ejemplo en vez de estar la agencia vasca de cooperación en lehendakaritza hubiese estado en políticas en el departamento de políticas sociales

al departamento de políticas sociales o hubiesen rebajado el cuarenta por ciento porque

eso es lo que usted no nos ha contestado aquí y eso es lo que ustedes del partido nacionalista y el gobierno vasco tienen que plantearnos y tienen que resolvernos aquí porque esa es la cuestión de fondo

y mire usted señora arregi la acción del gobierno

ha sido clarísima desde el año dos mil dos al año dos mil nueve

correspondientes a la cooperación en términos absolutos bajaron en términos relativos fue a partir del año dos mil diez

cuando se recuperó las cantidades relativas que se establecieron ya desde el dos mil dos y además mantuvo el incremento absoluto en cuanto aportación a la cooperación

del grupo socialistas vascos en esta comunidad autónoma eso es lo que podemos aportar aquí

qué van hacer a partir de ahora cómo van hacer esa recuperación porque decir que van a ustedes a querer es una cuestión de voluntad

que ustedes la concreten en nada nos dicen que quieren alcanzar los términos de cooperación al final de la legislatura pero no nos dicen cómo no nos dicen si este año es el cero coma treinta y dos el año que viene va a ser el cero coma cuarenta si este año destinan

creamos en su voluntad en conclusión

lo que tiene es un debe bastante importante muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

la votación por puntos de la enmienda transaccional a la que han llegado porque evidentemente estamos si votaríamos a favor del punto uno y tres porque tal y como dice el señor barrio

no nos incomoda hablar de cooperación mostrar nuestra voluntad a favor de la cooperación al desarrollo

alcanzar el cero coma cinco en el año dos mil trece y nos abstendríamos en el punto cuatro porque

que nos parece muy bien y como ya le he dicho y también le dijo el lehendakari cuando respondió a su interpelación

pero además de la coordinadora existe el consejo vasco de cooperación

que también son referentes en coordinación como pueden ser la universidad

a la coordinadora por lo tanto en ese punto nos obtendríamos si esto se permite la votación por puntos

barrio del partido popular agradecerle su tono su apoyo al gobierno su búsqueda en positivo de construir y de ayudar

ha llegado un poco tarde porque estábamos dispuestos a apoyar su iniciativa inicial que en realidad estábamos de acuerdo por lo tanto ese apoyo

lanzando también nos gustaría que en ese apoyo nos diga de dónde

no aplican ahí donde gobiernan pretenden aquí nos subimos todos al carro

a más dinero para cooperación respecto a la señora urrea de eh bildu

mucho antes de que incluso usted naciera el partido nacionalista vasco ya apostaba por la cooperación al desarrollo

y lo va a seguir haciendo así que no creo que nos pueda dar ninguna lección en este sentido me hablaba de unos presupuestos basados en el capital que es el

he de recordarle que son los presupuestos más sociales de la historia en los cuales siete coma cinco euros de cada diez

a servicios públicos esenciales me ha hablado también de las condiciones laborales de las y los trabajadores

como ya se le comento también un problema en el que se encuentran muchísimas

tampoco podemos obviar que las organizaciones no gubernamentales y esto se lo hemos dicho en privado y públicamente a la coordinadora también a la comparecencia que hizo en la comisión dependen en más de un cincuenta por ciento de su presupuesto

esta contradicción a nuestro entender que es admitida por la propia coordinadora y que reconocen que tienen que darle una vuelta al tema pero no terminan de hacerlo y no terminan de tomar ninguna decisión al respecto lo cual creemos que también deberían de darle

espinoso en cuanto al partido socialista señor unzalu no le voy a permitir que nos dé ninguna de ética dice que yo me he ido por los cerros pero usted no me ha contestado a ningúna de las cuestiones que yo le he planteado y sí tienen muchas cosas en el debe como ya le he explicado nosotros hemos dicho que vamos a recuperar los montos actuales a lo largo de la legislatura en ningún momento he dicho yo en esta tribuna ni dijo

en esta legislatura ojalá ojalá pudiéramos porque la situación lo permita

ojalá evidentemente el que gobierna decide dónde se encuadra la agencia vasca de cooperación y el hecho de que esté

a nuestro entender lo que hace es poner en valor la importancia de dicha agencia puesto que le da ese carácter de transversalidad bajo el amparo del propio lehendakari en cuanto

maneiro de upyd ha dicho que los recortes que se han practicado que son aquí

hace falta más que le eche una ojeada a los recortes practicados en otras comunidades autónomas y verá que en absolutamente todas se ha recortado

que nuestra apuesta por la cooperación sigue siendo y estando intacta que vamos a recuperar los montos

es una obligación legal aprobada por ley la ley vasca de cooperación que se aprobó en este parlamento en el año dos mil siete besterik ez eskerrik asko eta puntuka

presento en nombre del grupo popular esta moción consecuencia de la interpelación que presentábamos en el último pleno de control en relación con la redacción y tramitación de los expedientes de designación de las zonas de especial conservación las llamadas zec en nuestracomunidad autónoma y especialmente en álava el anterior gobierno

y gestión pertinentes como ya puse de manifiesto en la interpelación en la observación de los documentos elaborados

tanto de la sierra de entzia o robledales de la llanada o del río zadorra sorprenden varios aspectos tanto jurídicos como técnico ambientales

que hay que identificar los distintos organismos implicados notificarles el inicio de estos trabajos enviarles los documentos iniciales

competentes que son y nos referimos principalmente a las diputaciones pero también a otros entes que operan en muchas de estas zonas de interés comunitario parzonerías ayuntamientos o juntas administrativas

propietarios particulares la realidad es que esta consulta previa no se ha hecho y el resultado es que los documentos elaborados presentan lagunas importantes y principalmente no designan los órganos de gestión para las medidas de conservación que se plantean generando un vacío importante la señora consejera efectivamente nos dijo que tanto los documentos referidos a la sierra de entzia como para el río zadorra se van a redactar de nuevo

nos parece muy bien pero nos parece imprescindible recalcar el respeto competencial e insistir en la coordinación interinstitucional imprescindible para el correcto funcionamiento

una gestión por encima de la que se está dando ya en los montes

con usuarios y propietarios y que fruto de su buena gestión hoy estos espacios reúnen las condiciones idóneas para ser considerados de especial conservación esta nueva gestión por encima de las habituales

innecesarios también otro aspecto que ponemos en nuestra moción

es la referencia que en las medidas de conservación propone

por ejemplo de la zec de entzia donde exclusivamente tratan de prohibir limitar o modificar las

y que en gran medida han permitido que lleguen al día de hoy en estupendo estado de conservación no se plantea ninguna medida limitación o condición de ningún tipo dirigida a proteger los espacios de uso no tradicionales o externos como pueden ser recalificaciones o reclasificaciones

infraestructuras viarias etcétera y como cuarto punto de nuestra moción hacemos referencia a algo que nos parece importante que se aclare o por lo menos poner de manifiesto que nos preocupa algunos planteamientos que se han hecho en los documentos y es la financiación de las medidas de conservación

descanse o pretenda descansar en el plan de desarrollo sostenible nos preocupa nos preocupa porque entendemos desde el grupo popular que nadie tiene que ver el objetivo del

que va dirigido totalmente aspectos ligados a las actividades agrícolas ganaderas forestales o de la pesca

y principalmente a generar economías complementarias a estas actividades y entendemos que no coincide en los objetivos ni en los espacios

con las medidas de conservación de la red natura dos mil por lo tanto nosotros creemos que la directiva europea hace una mención en su artículo ocho a la financiación y dice que se debe presentar en los documentos una estimación económica de la aplicación de las diferentes medidas de conservación

que permita cumplir con las obligaciones de protección de estos espacios para nada se menciona el plan de desarrollo rural nosotros entendemos desde el grupo popular que

funciones muy específicas muy concretas que efectivamente puede tener medidas para las actividades ganaderas que puedan desarrollar su actividad dentro de estas zonas pero nos da la impresión que el documento que se ha presentado a la información pública

se excede de manera muy amplia

como les decía hemos presentado la moción a la moción se han presentado enmiendas hemos llegado a un acuerdo a una enmienda de transacción y la voy a leer dice lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en los decretos para la designación de las

de las medidas de conservación propuestas efectuándose estas determinaciones de conformidad con lo establecido en la ley dieciséis barra mil novecientos noventa y cuatro de conservación de la naturaleza

el segundo punto décimos que en cualquier caso las medidas de conservación respeten las competencias de los territorios históricos en materia de montes considerando especialmente los trabajos

que el establecimiento y aplicación de las medidas de conservación se realice teniendo en cuenta el carácter positivo que las actividades silvopastorales han desarrollado tradicionalmente en estos ámbitos

hacemos referencia a la financiación diciendo que la financiación de las actuaciones previstas en los documentos de medidas de conservación de las zonas zec descanse principalmente en el sistema de cofinanciación comunitaria

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre este es el acuerdo al que hemos llegado y es lo que se pondrá a votación

soilik esaten da a la hora de gestionar las actividades silvopastorales hay que distinguir para nosotros y nosotras entre hábitats naturales es decir aquellos

en nuestro caso mayoritariamente los bosques y los hábitats seminaturales en los que la intervención humana es imprescindible para conseguir y mantener ese estado como es el caso de los pastos montanos

el respeto a las actividades silvopastorales que se dan en la actualidad deberá de ser muy distinta en unos o en otros casos

se han reducido prácticamente a la extracción de madera utilizando mayoritariamente especies exóticas

de la forma en la que se ha desarrollado durante las últimas décadas son evidentes por lo que no puede invocarse el respeto hacia esas prácticas perjudiciales en los documentos de las medidas de conservación de las zonas zec seguramente

de cincuenta y dos espacios protegidos con casuísticas diferentes y realidades diferentes y desde luego no es la misma realidad y no se puede aplicar esa misma realidad en todos estos espacios beraz

si integrar la financiación de natura dos mil en otras políticas comunitarias aplicables u optar por un fondo independiente

estaba discutiendo en el año dos mil cuatro en la unión europea

y las partes interesadas han puesto de manifiesto una patente división de opiniones a este respecto la mayoría de los estados miembros

mientras que las partes interesadas se inclinan a favor de un fondo especial para natura dos mil pese a las limitaciones que se han mencionado anteriormente la comisión considera que la integración es la mejor opción por las razones siguientes eta aipatzen ditu arrazoi guztiak beraz

andrea legebiltzarkideok arratsalde on la iniciativa que hoy nos presenta la señora lópez de ocariz

la podríamos denominar como una especie de moción preventiva si entendemos el ataque preventivo como aquella acción que se emprende con el objetivo real o figurado de repeler una ofensiva o una invasión que se percibe como inminente es claro que algo similar es lo que ocurre con la moción del grupo popular como digo la señora lópez de ocariz interpelaba al consejero hace quince días

o de las medidas de conservación para las zonas especiales de conservación en el territorio histórico de araba fundamentalmente aun cuando la señora lópez de ocariz hiciera referencia a una serie de cuestiones sobre la tramitación de los expedientes para la declaración de estas zonas zec este era el motivo fundamental de su interpelación

el gobierno no tiene ninguna intención o propósito de modificar el reparto competencial

dijo además que el departamento va a ser absolutamente respetuoso con las competencias establecidas en las diferentes normas

que ya se han creado grupos de trabajo entre el gobierno vasco y las diferentes administraciones con la intención de elaborar

la interpelante también específicamente hablaba de los grupos de trabajo celebrados con

y finalmente se comprometió la consejera incluso a corregir algunos errores que a juicio señora lópez de ocariz existe en la página web del gobierno

hace referencia a una agresión que no se ha producido y que la consejera ha manifestado que no se va a producir

en la que recogemos algo de sentido común que la actuación del gobierno de deberá ajustar a la normativa aplicable

existen también otros mecanismos para la defensa o los intereses competenciales de los territorios históricos que cuando entiendan que se produce una invasión competencial entre ambas administraciones existe otra vía para reponer el orden vulnerado que consiste en plantear una cuestión de competencia ante la comisión de arbitraje señora lópez de ocariz

de conservación a través de los sostenibles debemos decir que el vigente en la actualidad que ya fue aprobado por consenso entre las diversas administraciones ya contempla la financiación de algunas medidas propias de los espacios de red natura dos mil en cualquier caso

deberán ser abordadas en la próxima modificación que se realizará a partir del próximo año como usted bien sabe

y no se puede renunciar de antemano a utilizar un mecanismo que la unión europea contempla para financiar

y que también hemos recogido en la enmienda transaccional haciendo referencia

la comisión europea señala el fondo feder como una de las fuentes de financiación de la red natura dos mil y por eso no debemos

como digo es de sentido común y que pido al resto de grupos que la apoyen

y quizás de alguna de estas cosas que aquí estamos hablando si no hubiese dado la espantada y estaría en la comisión de la ponencia técnica

únicamente para decir que la transacción a la que hemos llegado los tres grupos firmantes dice lo que dice señor maeztu es verdad que los temas medioambientales podíamos ampliar mucho más los acuerdos y la literatura que escribimos en las enmiendas

y los grupos enmendantes hemos hablado únicamente de esos temas y es eso lo que vamos a firmar en las enmiendas es verdad que en política medioambiental hay muchas normativas legislativas que están obsoletas que podrían actualizarse y para eso estamos aquí los grupos parlamentarios en nuestras manos están los instrumentos políticos que esta cámara nos da para poder presentar iniciativas

y usted que es el más interesado nos planteará iniciativas de modificaciones legislativas pero a ver si en las próximas modificaciones que hagamos
su grupo parlamentario no abandona la ponencia nada más muchas gracias eskerrik asko rojo

sí gracias señora presidenta brevemente por aclarar algunos aspectos primero quería dar las gracias tanto al grupo nacionalistas vascos como al grupo socialista por la buena disposición para llegar a un acuerdo bueno el señor maeztu ha venido a oponerse y se ha opuesto

señor aldaiturriaga usted me decía que la moción es preventiva pero es que tenemos antecedentes entonces cuando en el dos mil diez el gobierno sacó los pliegos de condiciones para contratar los servicios especificaba claramente

el primer documento era identificar los organismos competentes en la gestión y las entidades implicadas y elaborar con ellos

y el gobierno parece tener buena voluntad se publica el esquema de cómo va el documento desde el inicio hasta que aprueba el gobierno y efectivamente en el inicio se pone notificación inicio de los trabajos a organismos implicados

y otras comunidades autónomas que pueden estar limítrofes eso dicen el esquema

y todos entendemos que es razonable se ajusta a la legalidad yo no sé lo que ha pasado desde el dos mil diez hasta ahora pero la verdad es que los documentos y la tramitación

ni este esquema ni las condiciones que se ponían en los pliegos de condiciones la voluntad del gobierno

creo que la señora consejera tiene voluntad pero

espero que dada esta experiencia no vuelva a pasar y la moción no es que es preventiva es que venimos ya de unos hechos que nos han dado lugar a que ahora tengamos que volver a hacer un trabajo que tenía que estar prácticamente finalizado y que lo tenemos que empezar de nuevo

no es consecuente de unos hechos que vienen dados y que esa es la cuestión

se debe hacer nada más muchas gracias

oso labur muy brevemente nosotros simplemente

nuestra enmienda a la propuesta originaria del partido popular creemos y seguimos creyendo

la red natura dos mil todas las zonas de especial conservación con un marco legislativo totalmente obsoleto es un error

ahora y lo hemos defendido siempre y lo seguiremos defendiendo

tema es quien está gobernando y que tiene la posibilidad de traer modificaciones legislativas tenemos una ley de conservación de la naturaleza del año noventa y cuatro que estaba regulando tres figuras de protección parques naturales biotopos y árboles singulares

la red natura dos mil sin desarrollar lo que es una red natura dos mil y una red coherente de protección de la naturaleza por no hablar de los corredores ecológicos etcétera por lo tanto seguimos desarrollando

un marco legislativo adecuado luego se nos llena la boca con el autogobierno pero en aquellas competencias que tenemos que desarrollar nada de nada

si para ustedes una manera de hacer técnica legislativa es coger una propuesta de ley de las juntas generales de álava que habla de prohibir el fracking en los parques naturales y tirando de ahí adecuar a la normativa europea

el defensor de la técnica legislativa pero desde luego como mínimo se me ocurre que es bastante chapucero hacerlo así de todas maneras tendremos ese debate irá

legislativa y tendremos el debate de qué es lo que se ha hecho con informe legal en contra en esa ponencia

no tiene más que mirar en la bancada de abajo a su derecha o a su izquierda ocho años de eusko alkartasuna en la materia dan como tiempo para suficiente para elaborar una ley de conservación de la naturaleza o una normativa adecuada

que mire a su entorno y no mire enfrente y a la señora

preguntaba que decía que qué había pasado del dos mil diez al dos mil doce pues ha pasado que ha habido un gobierno con su apoyo eso es lo que ha pasado

sabe usted que sobre esta materia hemos hablado largo y tendido sabe nuestra postura perfectamente

de lo que se queja usted ahora es que aparezcan en los planes de gestión aparecen cuestiones con las que no son de su gusto y

recuerdo son decretos aprobados por el último consejo de gobierno del lehendari lópez señora

hacer mejor y que esperemos que estos aspectos queden corregidos en los nuevos decretos de declaración de las zonas zec eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna

sí muchas gracias presidenta buenas tardes a todas y a todos seré breve porque la proposición no de ley que hemos planteado es de entender no porque sea un tema menor es un tema ciertamente importante se plantea la reivindicación de una serie de principios que nosotros consideramos básicos pero

muy sencilla de entender sobre todo y porque hay una enmienda transaccional entre la mayoría parlamentaria entre el partido popular partido nacionalista vasco

iniciativa surge como consecuencia del cambio de gobierno surge como consecuencia de que no nos fiamos de este gobierno en este asunto en concreto

como consecuencia de determinadas declaraciones de la consejera de educación algunas de las cuales nos pusieron en guardia y nos sonaron incluso a amenaza

en el modelo a y dijo también que el sistema actual referida al modelo basado exclusivamente en el castellano no es válido para garantizar un conocimiento práctico de las dos lenguas oficiales es decir como consecuencia de ello se pretende

vasco diseñar al parecer un nuevo sistema para aumentar el peso del euskera en el modelo a y como consecuencia de que no nos

como tampoco nos podemos fiar del resto de grupos como tampoco nos podíamos fiar visto lo que se hizo en esta cuestión del gobierno

muy clara para observar si efectivamente el resto de grupos y en concreto el grupo nacionalistas vascos eran capaces de firmar una transaccional

en la que proponíamos instar al departamento de educación política lingüística y cultura del gobierno vasco a que garantice la libertad de elección lingüística y que el castellano pueda seguir siendo lengua vehicular en la enseñanza para todos aquellos alumnos que así lo deseen cualquier reforma o modificación de o en los modelos lingüísticos deberá respetar

una enmienda transaccional inicialmente el grupo nacionalistas vascos nos proponía otra

mucho menos clara que esta pero finalmente ha accedido a firmar esta transaccional que paso a leer

conjugándola con el cumplimiento del objetivo previsto en la legislación vigente de desarrollar

la educación obligatoria y por otro lado proponemos instar al gobierno vasco a garantizar que el euskera y el castellano puedan seguir siendo lenguas vehiculares así como posibilitar la inclusión progresiva del inglés en el sistema educativo por lo tanto esta iniciativa tiene en nuestra opinión básicamente

lingüística algo que no se ha garantizado hasta ahora ha habido presiones ha habido recomendaciones entre comillas para instar de alguna manera a los padres y madres a matricular a sus hijos en un determinado modelo es decir hasta ahora no se ha garantizado

libremente puedan elegir el modelo que prefieren para sus hijos modelo a modelo b

modificaciones y mejoras en el sistema de modelos no tenemos ningún problema con ello pero sin que esto suponga desvirtuar el modelo a o convertirlo en cosa distinta por lo tanto el segundo objetivo es que el modelo a

y no se desvirtúe y tercer objetivo que el castellano y obviamente el euskera pueda seguir siendo lengua vehicular en la enseñanza

aprender castellano que aprender en castellano y nosotros queremos que este siga siendo un principio absolutamente fundamental y que se garantice este derecho que los padres y las madres puedan elegir para sus hijos en el que la lengua vehicular sea el castellano es un derecho constitucional y derecho básico que por lo tanto tiene que mantenerse en el tiempo y tiene que mantenerse en el futuro en fin estos eran los tres objetivos que nosotros queríamos poner encima de la mesa y solo me queda agradecer a los grupos que han formado esta transaccional

y agradecerles también el voto a favor de esta iniciativa nada más y gracias

muchas gracias señora presidenta y muy brevemente también para una vez más y como si fuese

algunas de las cuestiones que hemos venido defendiendo en los últimos años cosas tan simples como que los padres puedan tomar decisiones en relación con la educación de sus hijos decidir exactamente

nuestra normativa nuestro sistema educativo quieren y pueden educar a sus hijos en cuál de las lenguas

pueden sus hijos cursar la enseñanza y si efectivamente es factible hoy en el dos mil trece que en euskadi

de sus hijos pueda tener una presencia suficiente en la escuela que la lengua materna de nuestros hijos

eso es algo que nosotros hemos venido reclamando desde hace muchísimos años que en muchas ocasiones hemos traído nosotros aquí hoy lo hace upyd y lo hace yo creo que con el objetivo

lo hemos puesto de manifiesto en este texto de transacción con el objetivo de buscar un acuerdo un acuerdo que nos tiene que llevar a todos a comprometernos

con un camino que tiene que ser el de respeto a las diferentes opciones de las familias a que desde la administración se trate de dar respuesta a

condicionar su elección condicionar su libertad que la administración

a través de los instrumentos que tiene a su alcance de los procesos de matriculación también la planificación educativa el mapa escolar tratar de introducir mecanismos que faciliten ese ejercicio efectivo a la libertad de elección de las familias eso es lo que nosotros

a la administración educativa creo que hoy una vez más tratamos aquí con este texto de comprometer al gobierno en esa dirección comprometer al gobierno

sino que mientras nuestro sistema educativo cuente con tres modelos

el b y el quinientos se respete la decisión de las familias no se coarte ni se condicione la elección

el derecho de las familias a elegir pero que además en un momento en el que tenemos que ir avanzando hacia un planteamiento trilingüe de la enseñanza

y que desde luego nosotros reclamamos desde aquí una vez más una apuesta por el inglés

una apuesta por el inglés que tiene que ir acompañada de un consenso básico

el tratamiento de las lenguas en la escuela y el tratamiento de las lenguas en la escuela para los próximos años no puede estar acogotado por los planteamientos de principios de mil novecientos ochenta y nosotros

que hay que mirar al futuro hay que mirar al futuro respetando el marco que tenemos pero hay que mirar al futuro sabiendo que tenemos que

respetando la autonomía de los centros e incorporando la posibilidad de que cualquier

el euskera y pronto cuando tengamos la oportunidad de tener un profesorado capacitado para enseñar en inglés el euskera el castellano y el inglés

las tres lenguas como lenguas vehiculares de la enseñanza de nuestros hijos ese es el objetivo pienso que tiene que ser

para los próximos años y a partir de aquí defender no solo la libertad de las familias y no solo que nos fijamos en este texto que los jóvenes vascos cuando terminen su etapa educativa puedan desenvolverse de una manera práctica suficiente en euskera castellano y en inglés ese tiene que ser un objetivo básico de nuestra de la escuela pública de la escuela concertada el gobierno el departamento de educación tiene que poner en marcha todas las medidas y también todo el esfuerzo presupuestario

tenemos una oportunidad para recorrer juntos este camino yo creo que apartando a un lado las disputas partidistas

somos capaces de respetar que

oficiales de nuestra comunidad el euskera y el castellano son las dos lenguas que las familias pueden elegir como lengua vehicular de la enseñanza puesto que siempre el sistema educativo

tenga una presencia suficiente en la escuela ese es el objetivo que perseguimos con esta proposición no de ley y
desde luego también nos felicitamos por el acuerdo muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

gaur baino lehen erretiratu ez izana la enmienda presentada por el grupo euzko abertzaleak se fundamenta básicamente en dos normas en vigor por un lado el artículo seis punto uno del estatuto de gernika que dice que el euskera

carácter de lengua oficial en euskadi además dice que las instituciones de la comunidad autónoma teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística del país garantizaran el uso de ambas lenguas regulando su carácter oficial y arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento

diez barra mil novecientos ochenta y dos de normalización del uso del euskara handik urtebetera mila bederatziehun eta laurogeita hiruan

ohiko tresna izatea nuestro grupo entiende que el gobierno vasco tiene que seguir conjugando cuatro principios como ha venido haciendo hasta ahora el primero es el relativo a la libertad de los padres y las madres a elegir la lengua de enseñanza

y que nuestro sistema garantiza el segundo tiene que ver con la enseñanza obligatoria de la lengua oficial que no haya sido elegida como vehicular el tercer principio a seguir debe ser el cumplimiento del objetivo de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales y el cuarto y no por ello el menos importante

internas como externas en los centros educativos aspaldi adostu genituen printzipio horiek

esan zituen hainbat gauzetan dago berak adierazi zuen es evidente que tenemos que aumentar el número de horas destinadas al euskera en el modelo a

por parte de las familias en la elección del modelo lingüístico gure ikuspuntutik legeak ezartzen dituen helburuak lortzeko ereduen

la firma de esta transaccional y el voto favorable insisto en que nosotros no nos fiamos del gobierno vistos los precedentes en los últimos tiempos se han aplicado políticas lingüísticas de imposición y se han cometido abusos para imponer

y denigrar el modelo a esta es nuestra opinión esta es nuestra experiencia esto es lo que hemos visto y nosotros como grupo que está en la oposición está en la obligación de insistir en esta materia y lo seguiremos haciendo mientras

este gobierno pueda ir por otros derroteros a los que aquí se plantean lo cierto es que ni siquiera el partido socialista de euskadi

pudieron hacerlo por esto es por lo que hay días de la marmota en este parlamento si esto se hubiera solucionado no estaríamos otra vez hablando de este asunto

desde los sectores nacionalistas se nos dice que el modelo a tiene poca demanda nosotros en fin no podemos olvidar que la reducida matriculación

es también consecuencia de por un lado la presión que se ha ejercido sobre las familias para que no elijan ese modelo y por otro lado la excesiva exigencia de conocimientos lingüísticos para acceder a cualquier puesto de trabajo de la administración que insisto ha hecho que muchas familias se hayan sentido presionadas para matricular a sus hijos

y nosotros pensamos que hay que eliminar también estas imposiciones para que haya libertad plena se nos dice desde los sectores que más temen

en eh bildu se dijo durante la comparecencia de la consejera la semana pasada se ha vuelto a plantear hoy incluso

me lo ha dicho hace escasos minutos en la calle se nos dice manteniendo el modelo a se priva a los alumnos del derecho que tienen a aprender el euskera

y ante esto hay que recordarles otra vez que la gente elige el modelo a porque quiere

por encima de todo no se puede decir que el modelo a discrimina

del derecho que tienen a aprender el euskera cuando son las familias los que eligen ese modelo hay muchas familias que eligen ese modelo y por lo tanto

en mayúsculas lo que hay que garantizar y defender en fin

alegra que hayamos llegado a un acuerdo pero estaremos vigilantes si esto que hemos firmado no se cumple insisto

y nosotros lo que vamos a defender son tres principios fundamentales que se garantice

que no se desvirtúe el modelo a y que el castellano pueda seguir siendo lengua vehicular justo lo que eh bildu quiere derrumbar y por lo tanto nuestra obligación es

al grupo parlamentario nacionalistas vascos y al gobierno para que acceda a impulsar las medidas que el resto de grupos defendemos esta es la obligación

iniciativa ya digo seguiremos vigilantes y seguiremos presionando al gobierno para que haga valer estos principios insisto porque hay otro grupo parlamentario que no comparte estos principios en absoluto que quiere acabar con el modelo a y que quiere imponer el euskera en la enseñanza a todas las familias sin excepción y a todos los alumnos sin excepción y ante este hecho

como grupo es presionar al gobierno para que estos principios que nosotros consideramos fundamentales sean aplicados finalmente insisto agradecer a los grupos

ya hablábamos de estas cosas antes de que llegase usted a esta cámara como

de conocer leyendo los diarios de sesiones porque ha traído aquí iniciativas prácticamente calcadas de las que trajo en su día

usted ya sabe que de estas cosas hemos hablado ya muchas veces y es verdad que tenemos que seguir defendiendo

las cosas no solo tienen que ver con los instrumentos que utiliza la administración sino con

con un problema que tiene que ver también que es un problema de fondo que ha llevado a muchas familias en nuestra comunidad que efectivamente si sus hijos no se matriculan en el modelo quinientos pues van a ser

campañas lideradas por determinadas asociaciones en muchos centros educativos tratando de arrinconar y de perseguir llamando analfabetos a los

los datos de las evaluaciones externas nos han llevado a conocer que los jóvenes

están entre los que obtienen los mejores resultados en la enseñanza en el país vasco luego

el problema sino que efectivamente aquí hay un problema de libertad y de los que efectivamente no quieren respetar

y la administración tiene que responder y tiene que cumplir con su obligación

defender juntos un planteamiento de modelos el que tenemos que yo le recuerdo que viene de los ochenta u otro que podamos compartir consensuar

pero en todo caso un planteamiento adecuado a los tiempos que no tiene por que sé una foto fija del modelo a que se planteó en el año mil novecientos ochenta y dos o en el año mil novecientos ochenta y tres sino que nosotros

en relación con la presencia vehicular de cualquiera de las dos lenguas oficiales si podemos hacer más atractivo para las familias el modelo a reforzando el euskera

por qué no se va a reforzar la presencia del euskera en el modelo a si

conseguimos hacerlo más atractivo para muchas familias en el país vasco y conseguimos que si bien el modelo a es elegido por miles de familias

pero en cambio estamos viendo como en infantil y en primaria las familias están optando mayoritariamente por los modelos b y quinientos porque quieren que

puedan alcanzar un conocimiento práctico del euskera suficiente e importante por qué no hacemos del modelo a algo más atractivo para las familias con mayor presencia del euskera sí por qué no no tenemos que tener miedo a eso

ir incorporando con una mayor presencia el inglés también en el modelo

igual que hemos conocido que ikastolas privadas concertadas en determinadas comarcas de bizkaia y de gipuzkoa refuerzan el castellano porque

y saben perfectamente reconocer cuáles son determinadas carencias y esas ikastolas concertadas hoy están reforzando carga horaria de castellano

igual hay que reforzar de alguna manera también el castellano y por qué no buscamos

que nunca se respetaron a la hora de establecer el mapa escolar durante tantos años por qué no buscamos el equilibrio para hacer de estos modelos

y a la propia también a la propia decisión de las familias hagamos de los modelos algo más atractivo o si vamos a superar ese esquema de modelos de los ochenta busquemos modelos que hagan compatible esos principios que usted ha dicho defender aquí y hagámoslo

que el propio usuario hay una evolución social por la cual

eligen sus modelos lingüísticos vigentes eligen el modelo y desde luego vamos viendo como las personas van asumiendo

puede sumar cuestiones que a lo mejor no tiene en determinado momento el modelo a en la enseñaza obligatoria vamos a hablar de la enseñanza obligatoria señor maneiro realmente usted sabe que

teológico de tirso de molina el condenado por desconfiado

usted firma con nosotros pero al mismo tiempo desconfía de absolutamente todo lo que hemos venido haciendo dice los gobiernos

que no haya habido campañas con eso con la religión y con otras muchas cuestiones que usted conoce pero

de ir hacia un modelo ha podido ir al modelo

por sí mismo el sistema de modelos confirma

la confirma otra cosa es que usted pretenda casar todos los indicadores centro modelo aula

la política lingüística ha de ser democrática y por lo tanto opinable desde luego ni la imposición franquista hizo desaparecer el euskera

presente o futura va a condenar el futuro del euskera de ninguna de las maneras en estos veinticinco o treinta años

lingüística es paradigmática es significativa y es modélica miles de hablantes se han incorporado al euskera en estos veinticinco o treinta años de tal manera

una situación lingüística de un país parte del punto del que se partía aquí con un ochenta por ciento de personas

una tarea de normalización del uso del euskera y ustedes pueden repasar los debates que hubo precisamente en torno

si ustedes repasan los debates las previsiones las más optimistas

a los sesenta y cinco o setenta años en treinta años hemos conseguido resultados

a ver gracias a quién a la escuela la escuela ha trabajado de manera impresionante de manera significativa ha sido un modelo de éxito a la hora de recuperar el euskera y por lo tanto yo creo que no conviene no conviene

por el euskera no conviene establecer modelos de imposición conviene adhesión diálogo escuela procurar incentivos y esto es lo que venimos haciendo mire usted parece que era muy sencillo

pero si ustedes se fijan un poco más lo que pasa es que estamos todos muy atareados observarán

se habla de modelos lingüísticos y se hace de una manera

consciente porque el sistema de modelos lingüísticos efectivamente en la enseñanza obligatoria está totalmente superado por la realidad

están todo el tiempo sin introducir una palabra en castellano más que las tres horas obligatorias eso no es verdad

es mentira afortunadamente afortunadamente no hay pantallas de cristal los modelos son flexibles y la realidad en manos de los profesionales es muchísimo más rica que lo que los modelos estancos marcan por lo tanto estamos en disposición y está es la importancia de este debate hoy esos dos párrafos tan sencillos

de empezar a pensar en cosas más serias con respecto al sistema de modelos por lo menos en la enseñanza obligatoria y a mí me parece que para eso señor maneiro señores señorías todas me parece que este ha sido un buen aperitivo para empezar a entrar en cosas más serias con respecto a la enseñanza obligatoria porque efectivamente el sistema de modelos en la enseñanza obligatoria está superado afortunadamente por la realidad

bai eskerrik asko legebiltzarburua señor maneiro la sociedad vasca ha evolucionado muchísimo más que sus planteamientos

normalidad sin traumas en positivo y pensando en el porvenir de sus hijos e hijas el otro día nos decía que no entendía cómo habiendo familias en las que no saben euskera haya

hoy nos ha venido a decir básicamente lo mismo con algún otro ejemplo pero

no sepan euskera no quiere decir que no crean que es interesante útil beneficioso enriquecedor o

que sus hijos e hijas puedan aprenderlo y de ahí que opten por modelos distintos